se refleja en los objetivos alcanzados educación se ha garantizado el mantenimiento de la educación presencial con más

se ha reforzado el personal docente y de refuerzo en el servicio de comedor o transporte la educación presencial tiene una gran relevancia para la vida social

y se pudo poner en práctica al mes siguiente en el curso

servicios públicos y salud vivimos tiempos complejos para gestionar los recursos públicos es necesario un mínimo ejercicio de responsabilidad en su defensa

valoramos lo que tenemos cuando lo necesitamos la satisfacción y el orgullo ante nuestro sistema sanitario

debe ir unido al sentido de responsabilidad para reforzar la sostenibilidad del sistema y su credibilidad

ha seguido mejorando sus infraestructuras sanitarias así entre otras hemos puesto en marcha nuevos centros de salud en aiete donostia murgia y bilbao ayudas sociales se han reforzado significativamente con ciento setenta y nueve millónes de euros

se han visto agravados por los efectos de una pandemia que deja más desigualdad también entre países y continentes residencias se ha mejorado

el veintitrés de agosto alcanzamos un acuerdo entre todas las instituciones vascas para avanzar en un nuevo protocolo epidemiológico para el ámbito sociosanitario

me refiero a la hostelería el comercio y los alojamientos turísticos euskadi es la comunidad que más ha apoyado con medidas propias y extraordinarias a este sector

ha tenido continuidad en dos mil veintiuno y ha sido complementario a las medidas de ayuda de la administración española

incluyendo la aprobación este mes de una nueva línea de subvenciones

el ámbito de la cultura ha sido otro sector duramente afectado desde las primeras semanas activamos tres convocatorias

que habían visto su actividad interrumpida o menguada la inversión en ayudas especiales a la cultura asciende a casi diez millónes de euros empleo nuestro gobierno respondiendo al acuerdo de la mesa de diálogo social ha aprobado este martes una nueva prórroga de la ayuda adicional de ciento cincuenta euros al mes para las personas afectadas por erte

esta ayuda es complementaria a las ayudas estatales de los erte que se pusieron en marcha

igualdad este es un objetivo central de nuestro programa

destaco especialmente el trabajo conjunto para erradicar la lacra de la violencia contra las mujeres la puesta en marcha de recursos y servicios a las víctimas de violencia machista o el teléfono de atención permanente las bases para la recuperación y la transformación

pero hemos seguido trabajando con la vista puesta en el cumplimiento íntegro de nuestro programa hemos superado la primera fase crítica de resistencia para dar respuesta al ámbito económico y del empleo ahora bien somos conscientes de que nos encontramos ante un proceso de transformación global

de dos mil diecinueve estamos hablando de una profunda renovación un nuevo renacimiento

los presupuestos de dos mil veintiuno los más elevados de nuestra historia

han sido dos de los instrumentos fundamentales para dinamizar las inversiones y el empleo

un fondo extraordinario adicional de ciento ochenta millónes de euros para impulsar veinticinco proyectos tractores en las zonas de actuación preferente este proyecto da respuesta a una solicitud de esta cámara para ayudar a las comarcas de enkarterriak

son las más castigadas por las últimas reconversiones industriales y han sufrido más intensamente el impacto económico derivado de la pandemia

ha tenido especial significación el acuerdo alcanzado por unanimidad en el seno del consejo vasco de finanzas públicas celebrado el pasado quince de julio

diputaciones forales a los presupuestos de euskadi para el quinquenio dos mil veintidós dos mil veintiséis el veintisiete de julio el consejo de gobierno aprobó el proyecto de ley que ha sido remitido a este parlamento

con la nueva metodología en la relación con el estado cabe destacar los acuerdos alcanzados en la comisión mixta del concierto económico el veintinueve de julio entre estos acuerdos se encuentra el relativo a la estabilidad presupuestaria que nos dota de certidumbre en relación al horizonte de déficit y deuda estos acuerdos unidos a la recuperación de la economía vasca

para facilitar unos presupuestos expansivos con una fuerte componente de inversión pública reitero aquí mi ofrecimiento para analizar conjuntamente el proyecto presupuestario y poder avanzar en un acuerdo de cara

clave tanto para la recuperación como para la fase de transformación en euskadi hemos dado los primeros pasos para afrontar la triple transformación global

energético medioambiental y socio sanitaria lo hacemos desde el modelo de desarrollo humano sostenible dos mil treinta sobre cuatro pilares innovación sostenibilidad cohesión social autogobierno todo ello pensando en la persona

innovación nuestro compromiso es incrementar un seis por ciento de media anual

este año el incremento ha sido del nueve por ciento hemos aprobado el nuevo plan de ciencia tecnología e innovación dos mil treinta que contempla inversiones público privadas

consolidándose entre las cuatrocientos mejores del mundo la investigación científica recibirá un impulso con el refuerzo de ikerbasque y la estrategia

neurociencias tecnologías cuánticas neutrónica supercomputación e inteligencia artificial la investigación científica recibirá un impulso por lo tanto nuestro objetivo es situar euskadi como una región europea

hemos avanzado porque el último informe de la unión europea ha calificado a euskadi como región de alta innovación y polo de referencia en europa

la apuesta por la innovación del tejido productivo la internacionalización de la empresa o el alto grado de titulaciones universitarias

su competitividad y arraigo es fundamental en nuestro modelo económico en mayo nuestro gobierno autorizó la creación de la sociedad pública finkatze kapitala finkatuz

ampliable hasta los trescientos millónes representa un instrumento para facilitar la participación pública en el capital de empresas vascas tractoras y contribuir así

vamos a consolidar el centro vasco de ciberseguridad elegido

de un fondo europeo que tiene como objetivo potenciar la inversión en empresas de ciberseguridad este fondo cuenta con la participación de cuarenta y dos agentes

en abril presentamos el plan interinstitucional de emprendimiento dos mil veinticuatro con el reto de consolidar euskadi como un ecosistema atractivo para el emprendimiento

centro de investigación e innovación aplicada de la formación profesional de euskadi nombrado

europea estamos incorporando la innovación en el ámbito de las industrias culturales y creativas la cultura vasca

divulgación y proyección internacional como seña de identidad colectiva la cultura es un factor fundamental de integración cohesión y proyección de euskadi la cultura es un elemento para la inclusión también para la transformación social

el transporte ferroviario contribuye a la mejora de la movilidad y la reducción del impacto medioambiental se avanza en las obras previstas por eusko trenbideak

está pendiente de resolver el plazo definitivo para los accesos a bilbao y gasteiz pero confío en que antes de finalizar este año alcancemos un acuerdo

cualquier posibilidad que no suponga una demora en el calendario establecido toda esta actividad se orienta a favorecer la creación de más

con este objetivo hemos iniciado un proceso de renovación y reforma de lanbide para potenciar su carácter de orientación intermediación y sobre todo inserción laboral hemos aprobado la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que aborda el reconocimiento del derecho subjetivo a la formación y la activación laboral

de la mejora del empleo y del acuerdo tripartito entre administración agentes sociales y económicos este martes hemos firmado cinco acuerdos en materia de transición digital justa

formación profesional igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial

y nuevos nichos de empleo estamos mejorando e innovando también en el diálogo social innovación

empleo inversión y diálogo social son las claves fundamentales de este primer pilar de transformación reitero nuestra disposición a avanzar desde el diálogo

a más autogobierno más posibilidades de prosperidad más sostenibilidad y más políticas sociales autogobierno es sinónimo de bienestar

comienzo por subrayar que este año hemos realizado una propuesta a la conferencia sobre el futuro de europa a través de la carta de las regiones con competencias legislativas las y los dieciséis firmantes planteamos una transformación institucional desde la participación entre otras de las firmantes cataluña valencia o baleares flandes tirol o salzburgo

de la unión europea es importante participar en esta visión sobre el futuro de europa hoy este futuro suscita más interrogantes que respuestas

a pesar de los desencuentros puntuales y los momentos de estancamiento la unión europea viene configurándose como un proyecto de paz libertad y justicia social

como un espacio de bienestar y compromiso social que apuesta por la cooperación es prioritario que la unión europea asuma un mayor protagonismo como actor global

con este espíritu vamos a aprovechar nuestra presidencia para dar un impulso al proyecto de la eurorregión nueva aquitania euskadi navarra

y vamos a relanzar los ámbitos de trabajo de la economía del conocimiento formación y universidad euskampus innovación competitividad empresarial

cultura y turismo asimismo vamos a impulsar una gobernanza transfronteriza renovada y una estrecha colaboración con la mancomunidad de iparralde

el proyecto de eurorregión es básico para lograr una mayor inversión de la unión europea en el corredor atlántico debemos lograr una mayor atención de las instituciones comunitarias

como espacio de desarrollo colaboración progreso económico y social defendemos la creación de una macrorregión atlántica que permita responder mejor a los retos planteados la estrategia marco de internacionalización

es la base para reforzar la red institucional propia en el exterior intensificar la participación directa en las redes internacionales tejer una comunidad vasca global así como fomentar la colaboración con los agentes sociales económicos y culturales siguiendo con el autogobierno y en el marco de la relación bilateral con el estado en febrero mantuve una reunión con el presidente del gobierno español con el objetivo de abordar la gestión de los fondos europeos y el calendario de trasferencias pendientes entre otros temas fruto de este encuentro

en mayo se reunió la comisión mixta de transferencias para aprobar el traspaso a euskadi de cuatro materias pendientes entre ellas la gestión de centros penitenciarios tenemos mucho camino que recorrer para dar cumplimiento al autogobierno reconocido

en función del calendario acordado en el ámbito de la gobernanza colaborativa y la bilateralidad el dieciocho de junio se celebró la primera reunión en cuatro años

y su acceso a organismos internacionales para que pueda realizar labores de vigilancia en los veintiséis países de la zona schengen en marzo y julio se han celebrado

en las que se aprobaron importantes acuerdos en materia de autogobierno económico y fiscal la concertación del impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre servicios digitales así como la adaptación del concierto al nuevo sistema de iva para el comercio electrónico

estos acuerdos suponen además la consolidación del concierto económico también en los impuestos de carácter internacional por último se ha realizado con éxito la quinta emisión del bono sostenible euskadi

esta base de certidumbre económica presupuestaria financiera y fiscal nos permite desarrollar una gestión responsable de las finanzas públicas en favor de la sostenibilidad

el arraigo empresarial y el empleo reitero nuestra disposición al diálogo sobre la base del documento de directrices económico presupuestarias de cara a la negociación de los presupuestos para el ejercicio dos mil veintidós segunda parte resultados

he expuesto las principales actuaciones del gobierno en su primer año de legislatura coincidiendo con la lucha contra la pandemia innovación sostenibilidad cohesión social y autogobierno son los valores

soy consciente de la tormenta que estamos atravesando consciente de las sombras de este primer año

consciente de que tenemos un gran recorrido de mejora autocrítica humildad y espíritu de mejora continua estas son las claves de nuestra gestión

el gobierno ha mantenido las luces largas que nos han permitido sostener el rumbo a pesar de la tormenta

afortunadamente mantenemos la dirección y los objetivos para esta legislatura los resultados obtenidos en los diez objetivos de país son la referencia de una gestión comprometida con la rendición pública de cuentas

primer objetivo de país reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento la tasa de paro referida al segundo trimestre de este año publicada por eustat

en agosto de dos mil diecinueve la cifra de personas afiliadas a la seguridad social

en agosto de este año han sido de novecientos cincuenta y tres mil esto es

en este mismo periodo el número de personas paradas registradas fue de ciento dieciséis mil hace dos años

estamos cerca de recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia

hoy representan el treinta y ocho coma cuatro por ciento de nuestra riqueza

han lastrado el empuje de este sector en todo caso en agosto de dos mil veintiuno

el veinte de julio aprobamos el plan estratégico de desarrollo industrial e internacionalización

y el reto de consolidar la industria como motor de la economía vasca

en línea con la media europea somos la comunidad autónoma que más recursos destina

y nuestro compromiso es mantener un crecimiento anual superior al seis por ciento hasta dos mil treinta cuarto objetivo colocar euskadi entre los cinco países europeos

el sexto puesto posiblemente la pandemia ha incrementado las diferencias sociales y debemos redoblar nuestro compromiso en todo caso según eustat el gasto en protección social por habitante en euskadi se sitúa en ocho mil novecientos euros

y un treinta y nueve por ciento superior a la media del estado nos encontramos entre los tres países europeos con menor tasa de pobreza según eurostat

quinto situar euskadi entre los países europeos con mayor índice de igualdad de género esta es una meta comprometida y exigente sí pero también ilusionante

en el índice del instituto europeo de igualdad de género no estamos satisfechos queremos seguir avanzando en este compromiso el proyecto de la nueva ley de igualdad aprobado el mes de noviembre y en tramitación parlamentaria constituye un acicate para seguir avanzando en la igualdad y combatir mejor la violencia machista

comienzo por afirmar que la erosión competencial del autogobierno transferido es tan grave como el contumaz incumplimiento del autogobierno reconocido

ha publicado el libro la erosión silenciosa este informe constata y documenta que las invasiones competenciales que ha sufrido euskadi en las últimas décadas

más allá de la relación de materias pendientes es preciso señalar una realidad de gran calado e impacto

da la sensación de que asistimos a una mutación progresiva de las reglas políticas de relación entre euskadi y el estado que parecen perseguir una nueva relación más uniformizadora

por todo ello progresar en autogobierno no es solo conseguir las transferencias pendientes es también volver la vista atrás para asegurar

y sigue suponiendo el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco singular

y constituida por la titularidad de los derechos históricos en segundo lugar me centro en el autogobierno reconocido y pendiente de transferir el autogobierno es el núcleo central de nuestro proyecto para euskadi en esta cámara compartimos el objetivo del cumplimiento íntegro

en enero de dos mil diecinueve el gobierno español acordó por primera vez un compromiso para culminar todas las transferencias pendientes además para octubre del año pasado debía estar transferida íntegramente la competencia con respecto al ingreso mínimo vital

el gobierno vasco mantiene la determinación de avanzar en este cronograma

jurídico y también político en tercer lugar me refiero al autogobierno necesario en esta cámara compartimos de forma mayoritaria la necesidad de profundizar en el autogobierno adaptado a la nueva realidad de la unión europea y en el marco de un modelo territorial del estado que precisa

y ha hecho posible dar continuidad a la institucionalización de euskadi nos ha permitido alcanzar el grado de progreso bienestar y justicia social con que contamos

se trata ahora de pactar la modernización de esa forma de relación singular y bilateral

la actualización de los derechos históricos debe abarcar un mecanismo de bilateralidad efectiva autogobierno es pacto y conecta

en un debate de política general he afirmado que euskadi es una nación foral

es singular somos un país plural planteo una mirada al futuro desde la realidad histórica

hace ciento cuarenta y cinco años se promulgaba y sancionaba la ley de la abolición de los fueros

el marco jurídico político en que habíamos vivido los territorios vascos se finiquitaba el peculiar sistema democrático representativo que venía ya condicionado por la fórmula cito sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía

ahora nos encontramos ante la oportunidad de alcanzar un nuevo pacto que reconozca nuestra realidad nacional

asiente una relación bilateral con el estado y favorezca la presencia y proyección internacional de euskadi la actualización del autogobierno entronca con un arraigo más profundo en los derechos históricos que ampara y respeta la constitución

encomienda la actualización general de ese régimen foral al estatuto

que no fue en realidad un privilegio sino una imposición a raíz de la abolición de los fueros se plantea como un punto de referencia eficaz

apelo en primer lugar a una mayor defensa pública del modelo de concierto económico

por una extensión de este mecanismo de éxito a una nueva fórmula de concierto político vasco es decir lealtad recíproca y seguridad jurídica en el ejercicio de un autogobierno actualizado con el objetivo de desarrollo individual y colectivo un autogobierno vertebrador una fórmula de concierto político que dé respuesta a la conciencia social mayoritaria y contribuya a resolver el denominado problema vasco una fórmula de concierto que en cumplimiento de la disposición adicional única del estatuto la disposición adicional primera de la constitución y la disposición derogatoria segunda de la constitución nos permita

y retornar a la soberanía anterior a mil ochocientos treinta y nueve una fórmula de concierto que consolide un sistema político de convivencia

estableciendo un instrumento que preserve la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado la base es un sistema concertado que impida la modificación unilateral del nuevo pacto político alcanzado este parlamento es

el diálogo y el acuerdo político tenemos la oportunidad de culminar el trabajo desarrollado por la ponencia de autogobierno planteo

alcanzar en esta cámara un consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno este consenso debe permitir materializar el deseo mayoritario de la sociedad vasca concretado en una actualización y profundización de nuestro autogobierno esta es una base compartida para avanzar en el relanzamiento de euskadi de la nación vasca la nación de la igualdad la solidaridad la cohesión social el progreso

cuarta parte compromisos de actuación inmediata comienzo esta cuarta parte subrayando veinte compromisos prioritarios del gobierno para el presente curso al servicio del relanzamiento de euskadi uno

dos desarrollo de la nueva ley de igualdad tres plan de derechos humanos convivencia y diversidad udaberri dos mil veinticuatro cuatro

cinco aprobación de la ley de aportaciones y aplicación a los presupuestos dos mil veintidós seis

y programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y personas autónomas siete apuesta por las industrias culturales y creativas a través del clúster ksigune

ocho desarrollo del centro de inteligencia artificial de euskadi

nueve creación de la delegación de euskadi en parís y apertura de las oficinas

diez participación de euskadi en la cumbre mundial del planeta

consolidación del empleo en los servicios públicos esenciales especialmente salud y educación doce plan de renovación de infraestructuras en educación

trece extensión de la formación dual en colaboración con cinco mil empresas catorce

en la respuesta al reto demográfico incluyendo las ayudas directas a la natalidad quince reforma de la renta de garantía de ingresos dieciséis reforma de lanbide y nuevo sistema vasco de empleo diecisiete

dieciocho apoyo a la digitalización del sector turístico y comercial de euskadi impulso al comercio urbano de proximidad que da sentido a la vida de los pueblos

políticas de transición hacia un nuevo modelo de cuidados sociales y sociosanitarios veinte cartera de prestaciones del nuevo plan de salud

estos son nuestros compromisos para este mismo año están recogidos en nuestro programa y constituyen parte sustancial del contrato social

nos hemos comprometido a mejorar y modernizar los servicios públicos de la mano de la digitalización de la administración una administración moderna y eficaz transparente abierta a la participación ciudadana comprometida con la calidad la honestidad la mejora continua y el buen gobierno

son eje y objetivo de todas las políticas públicas de nuestro gobierno en esta línea con el objetivo del relanzamiento económico y del empleo presento una iniciativa inmediata que prepara el gobierno vasco para impulsar la inversión en euskadi se trata del plan de inversiones

los acuerdos alcanzados en el consejo de finanzas y en la comisión mixta del concierto nos ofrecen a todas las instituciones vascas una garantía de estabilidad en el ámbito fiscal financiero y presupuestario

nos proporcionan la oportunidad de impulsar un plan de inversiones generadoras de empleo el escenario previsto es de recuperación económica mundial las cinco componentes del sentimiento económico ofrecen una perspectiva favorable así

los servicios la construcción el comercio minorista y la confianza de las familias

y un cinco coma siete por ciento el siguiente este crecimiento permitirá alcanzar el nivel de actividad previo a la pandemia recuperando también los ingresos públicos en este escenario el plan extraordinario de inversiones comienza

y tendrá continuidad en la propuesta presupuestaria para dos mil veintidós el importe de este programa extraordinario será de doscientos cincuenta millónes de euros que se sumarán a los más de mil millónes que recogerá la propuesta de presupuestos

y a los fondos de recuperación y transformación que llegarán desde la unión europea la capacidad inversora total del gobierno vasco para el próximo año será de

la financiación del programa extraordinario en dos mil veintiuno proviene básicamente de remanentes de tesorería

esta capacidad adicional se destinará a cuatro prioridades de inversión infraestructuras sociales educativas socio sanitarias

y vivienda estos proyectos recogerán el cincuenta por ciento del programa infraestructuras económicas industriales tecnológicas y digitales su objetivo es intensificar la transformación y diversificación de la industria y los servicios avanzados

el objetivo es situarnos a la cabeza de las nuevas fuentes de energía renovable la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático infraestructuras de comunicaciones

en materia ferroviaria y portuaria este plan de inversiones ofrece una oportunidad adicional para materializar el espíritu de acuerdo y colaboración que he planteado ante este parlamento termino

un relanzamiento anímico y emocional después de una experiencia social familiar y personal tan dura y difícil como la causada por la pandemia

las lecciones aprendidas apelan a fortalecer los principios y valores que compartimos compromiso con las personas

euskadi bien común modelo de desarrollo humano sostenible y relanzamiento

el relanzamiento de euskadi requiere promover un estado de ánimo de superación y esperanza en un futuro positivo

anímico y emocional fruto del duro contexto que nos ha tocado vivir

la pandemia sigue ahí es cierto pero vamos logrando dejar atrás sus efectos más trágicos y devastadores en términos de vidas humanas y afección a nuestra salud

la primera y quizás la más importante es reconocer las limitaciones de nuestra capacidad de predicción en contextos de elevada complejidad

hemos debido aprender a gestionar la insatisfacción individual en la denominada sociedad insatisfecha una crisis de esta magnitud

el realismo y la ponderación en nuestras propuestas la segunda lección nos lleva a aprender de los errores cometidos en crisis pasadas

aquella crisis se caracterizó también por su impacto múltiple desde la economía pasando por la política hasta el terreno de la cultura y los valores

los errores en la gestión internacional de aquella crisis de dos mil ocho generaron problemas que aún hoy seguimos tratando de solventar especialmente la creciente desigualdad o la precariedad

y de la desconfianza hacia las instituciones en este sentido es urgente la articulación del equilibrio entre la sociedad civil organizada y unos marcos

observamos con preocupación cómo se abre camino en la sociedad la dicotomía entre eficacia y legitimidad democrática

es necesario y urgente reivindicar la defensa y mejora de los sistemas democráticos y representativos

hacer mención al auto del tribunal superior de justicia del país vasco del pasado martes sobre el aforo de los estadios en euskadi destacaré dos puntos

el respeto es una regla indispensable del funcionamiento institucional segundo desde el primer día nuestro empeño ha sido adoptar decisiones equilibradas

después del último auto vamos a seguir con este empeño la reunión que hoy celebrará la comisión científico técnica del labi y la que mañana celebrará

nuestra prioridad va a seguir siendo preservar el bien mayor de la salud pública berrikuntza jasangarritasuna